señorías el grupo socialista mantiene como voto particular a este dictamen la redacción original de los artículos setenta y setenta y uno de la proposición de ley planteada en octubre por este mismo grupo

porque los artículos setenta y setenta y uno

tienen como objetivo incorporar itsasmendikoi en su conjunto a la red de centros integrados de formación profesional de departamento de educación

por las siguientes razones primera porque el objetivo principal de estos centros es y debe ser formar profesionales del sector primario en materia agrario alimentaria y marítimo pesquera

al mercado de trabajo esto es profesionales con titulación o con certificados de profesionalidad y la titulación o la certificación de profesionalidad solo la pueden otorgar los departamentos de educación

y el del empleo en el caso de los certificados no ningún otro señorías el departamento de desarrollo económico y competitividad ni puede titular ni puede certificar profesionalidad por lo que

aquellos diplomas que otorgue con aquellos diplomas los usuarios no podrán acudir directamente al mercado de trabajo homologado tendrán que volver a pasar por las ventanillas de educación o empleo para su correspondiente formación

una duplicidad clarísima una molestia para el usuario cuando no un fraude

un despilfarro de recursos por parte de la administración

una disfunción una pérdida de tiempo para el alumnado y desde luego un gasto adicional para la administración señorías el propósito de la formación en sector primario es aumentar

y la ocupabilidad de los profesionales que se acerquen a trabajar en este sector les daré una segunda razón

toda la formación profesional europea vasca incluso y el resto del estado

una legislación única para la fp orientada en una sola dirección conseguir un sistema de fp que trabaje basado

para garantizar en todo momento la correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades
del mercado de trabajo isiltasuna mesedez denak se trata de configurar

como un único sistema superando aquella tradicional división entre formación profesional inicial reglada

y continua esta es la mirada antigua buscamos y trabajamos por una mirada nueva

que integre como les digo la formación profesional en un único sistema y la legislación vasca estaba preparada

itsasmendikoi en su conjunto e incorporarlo a la red

integrados para ello teníamos ya desarrollado un decreto desarrollo de la ley

primera ley de esta legislatura a propuesta socialista incorporarlo como digo en la red de centros integrados

de coordinar y relacionar con los distintos agentes tanto públicos como privados y ordenar un sistema integrado que articule la fp

esto señorías nos lo perdemos si no se aprueba el voto particular porque además dejábamos permitíamos que el departamento de desarrollo económico y competitividad competente en materia agraria alimentaria náutico pesquera etcétera

con su saber hacer para impartir las enseñanzas colaborando en las prácticas del alumnado para orientar los contenidos en las unidades curriculares

una tarea tiene una tarea que abordar el dictamen planteado hoy sin embargo fracciona como les digo la oferta educativa

antigua discordante con respecto a lo que hace el resto de centros de formación profesional con el resto de familias con el resto de sectores porque aparta separa la formación reglada

dejando una residenciada en el departamento de educación como se debe y otra

como no se debe por tanto el voto del grupo socialista será naturalmente

de no prosperar como ha ocurrido en comisión se convertirá en una abstención al dictamen de la ley porque si bien hemos conseguido una parte muy importante que no se habría conseguido

esté residenciada en educación la de que los centros estén

y los profesionales por lo tanto esta parte sí está lograda sin embargo nos queda trabajo por hacer y no lo vamos a abandonar

que con el tiempo habrá un convencimiento de las fuerzas políticas que hoy unen sus votos para votar otra cosa para votar la separación

en sector primario y algún día también se unirán a esta posición por lo tanto anuncio la abstención de mi grupo a este respecto esperando que lleguen un tiempo mejor que llegue un tiempo mejor para que todos los objetivos pretendidos que serán

para los profesionales del sector primario puedan verse aprobados por este parlamento nada más

ez da egongo en principio no hay un turno a favor pero maneiro también quiere un turno a favor ah me había parecido que habías dicho turno

principio hay explicación de voto pero bueno si quiere participar en el turno a favor luego explicación de voto no tendría baina no hay turno

turno a favor ez dago

se ha agotado el tiempo de turno a favor no de turno a favor sino la defensa de voto particular cinco minutos de la explicación de voto si quieres te los doy ahora

con su permiso señora presidenta siempre que hay un debate de enmiendas o de votos particulares tiene que haber un turno a favor y un turno en contra siempre

de las enmiendas en este caso votos particulares estará la votación de la proposición de ley o del texto que va a ser ley y entonces

participe en todos los procesos de esta actuación legislativa sería incomprensible vamos

buenos días señor lehendakari señoras consejeras señorías

de la modificación que se pretende con esta proposición de ley y que coincide plenamente con lo en esta cámara en el debate de la moción que desde el grupo popular presentamos referente al futuro de la formación agraria y náutico pesquera de la comunidad autónoma del país vasco donde esta cámara aprobó

con cuarenta y ocho votos a favor y veintiséis en contra en la que este parlamento instaba al gobierno vasco a situar la formación agraria
y náutico pesquera no puedo seguir jarraitu mesedez

esta cámara aprobó una enmienda de transacción con cuarenta y ocho votos a favor y veintiséis en contra en la que este parlamento instaba al gobierno vasco a situar agraria y náutico pesquera en el departamento de educación política lingüística y cultura realizando las modificaciones legales

lo que queremos señorías es una formación agraria y náutico pesquera

como la formación para el empleo con mayúsculas una formación de igual calidad al menos que el resto de la formación profesional

lo que habitualmente se ha venido haciendo de manera

que queremos una formación agraria que sea de calidad y respetando a aquellos que deciden hacer esa formación no

engañando porque no puede dar el departamento de desarrollo económico y competitividad los certificados que da educación por lo tanto estamos de alguna manera engañando a aquellos que acceden a este tipo de formación

a la proposición de ley que presentó el grupo socialista porque como digo compartimos plenamente los objetivos que plantea esta proposición que repito son la formación reglada encaminada a titulaciones su competencia y su gestión

competente en educación y que la formación para el empleo encaminada a la certificación y capacitación recaiga en el departamento competente en formación para el empleo de la comunidad autónoma del país vasco y compartíamos las modificaciones y compartimos el articulado propuestos y por eso

los votos particulares que la señora celaá ha presentado aquí porque entendemos que es lo mejor para la formación agraria para la formación completa vistas las enmiendas de los otros grupos el grupo nacionalistas vascos mantiene su criterio de dejar todo como estaba cómo no eh bildu

más de matiz y ampliación de criterios pero no enmendaba los objetivos en el debate de las enmiendas eh bildu ha cedido aparte de las pretensiones del grupo nacionalistas vascos y ha conseguido el pnv que eh bildu

en parte de los objetivos de esta proposición de ley el que afecta a la formación para el empleo que se proponía

se pierde una gran oportunidad para poner la formación agraria

como les decía al mismo nivel que el resto de la formación profesional

se rompe el carácter específico de centros públicos de formación profesional integrados que permiten ofrecer y prestar otros servicios como la formación para el empleo la formación profesional en el país vasco goza de un

y que ha demostrado el buen hacer de los centros de los profesionales todo ello desde el paraguas de la educación y de la interrelación con los sectores productivos vinculados por lo tanto cuál es el miedo del grupo nacionalista vasco la formación no el miedo no es la formación esa no es su preocupación su preocupación es no perder la tutela

que ha venido ejerciendo en estas escuelas agrarias y náutico pesqueras tiene miedo tiene vértigo no piensa en unos buenos profesionales piensa en seguir mangoneando y qué hace eh bildu dando un giro de ciento ochenta grados en el último momento de momento permitir

lo que el señor lazarobaster nos debería de explicar cuál es la contrapartida formar parte del chiringuito tal vez señor lazarobaster
esto que denunciaba hace poco más de un año cómo ha cambiado señora celaá eskerrik asko lópez de ocariz andrea denbora agortu zaizu

erderaz que no le entiendo se le ha acabado el tiempo eskerrik asko gracias muchas gracias kontra

tiene derecho a explicación de voto y sino vamos a ver la tramitación en relación con lo que

debate de votos particulares votaciones y explicación de voto

es una indefensión en cualquier caso esta situación que se crea por parte de la presidencia del parlamento vasco en la ordenación de este debate parlamentario

presentado y mantenido por el grupo socialistas vascos y ahora tiene derecho a la explicación de voto en relación con el conjunto del dictamen el conjunto de la proposición de ley en conjunto de proyecto ley

luzeagoa da todo empezó en mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y dos cuando el estado transfirió las competencias en formación agraria y pesquera al gobierno vasco

en que al hilo de la aprobación en este parlamento del primer plan estratégico rural vasco la formación agraria se ubicó en la empresa pública mendikoi y ya en dos mil seis

en el ámbito del departamento de agricultura y pesca todo iba bien

con una normalidad que para nada auguraba lo que se aproximaba ya en dos mil nueve por si ustedes no lo recuerdan el partido socialista se hizo con el gobierno vasco con la ayuda del partido popular

sin ningún debate sectorial y motivado exclusivamente por motivaciones de carácter sindical como reconoció la entonces consejera del ramo doña pilar unzalu

juridikoki legearen kontrako txapuza bat zen por si fuera poco el despropósito

los decretos que confirman el traspaso de la competencia y que modifica las estructuras de los departamentos correspondientes se aprobaron en la reunión del consejo de gobierno

le recordará que en ese mismo consejo de gobierno se convocaron las elecciones que abocaron en este parlamento actual el último día a última hora a prisa y corriendo

una disposición con rango de ley fue un bote pronto un queda bien con algún sindicato que el tema ni siquiera aparecía en el programa del partido socialista

y que consolidaba la formación en el área de agricultura y por tanto se supone que colaboraba con lo que vienen a llamar el mangoneo hortik aurrera

izango duela solo desde el pacto el acuerdo la conversación con los sectores

se puede avanzar en aspectos que continúen consolidados en el entramado administrativo solo desde un acuerdo se avanza y no desde un decreto unilateral ajeno al sector y en el último consejo de gobierno

más que la representante del grupo parlamentario socialista parecía a veces que teníamos a la exconsejera de educación del gobierno empeñada en sostener

la correcta y la sensata pues no ha oído

puede que esta le guste menos o que no la considere suya pero ha sido más negociada entre grupos y más trabajada

el sector ha participado en el debate y no solo los sindicatos de los trabajadores y tiene más mayoría parlamentaria que la que pudo haber defendido aquel decreto de última hora esta es menos suya

pero es un poco de todos y eso casi seguro es mejor ya lo dijo el psicólogo gustave le bon gobernar es pactar y pactar no es ceder yo le concretaría que nosotros hemos ayudado a gobernar

presenta hoy una proposición de ley para ayudar al sector audiovisual vasco

desde hace años una decadencia agravada por la piratería de sus productos por eso creemos que el pequeño impuesto que pretendemos aplicar a los operadores telefónicos es un acto de justicia que devuelve al sector de la producción cinematográfica y audiovisual de los costes de su trabajo para que puedan seguir produciendo en definitiva es una ayuda de justicia y fundamental para la supervivencia del sector y la garantía de que se cumple el derecho a la cultura en ese ámbito tengo que decir que esta iniciativa tiene el apoyo de los productores y también de los trabajadores y trabajadoras de este sector cámaras actores electricistas guionistas etcétera profesionales con trabajos cada vez más precarios

y por el abandono de la administración es cierto que otros muchos sectores tienen problemas en esta época de crisis pero en el caso de la producción audiovisual es necesaria

como restitución de lo que pierde por las descargas gratuitas y a esto se dirige esta iniciativa a reforzar la producción cinematográfica y audiovisual vasca sin detraer de los presupuestos públicos ni gravar a los consumidores financiándola desde el propio sector

y el caso es que los beneficios de su trabajo van a los operadores telefónicos que ofrecen cada vez bandas más anchas para la transmisión de datos por las que circula gratis para el consumidor la producción de la industria cinematográfica y audiovisual

por una parte el gobierno reduce sus ayudas al sector etb

y los operadores de telefonía facilitan la descarga gratuita de las producciones con lo que ellos aumentan sus contratos

se desmorona fíjense hasta qué punto eso es así que las ayudas a la creación desarrollo y producción audiovisual

se han reducido a menos de la mitad de la pasada legislatura a esta concretamente en dos mil catorce en un cincuenta y cuatro coma cinco por ciento

ha eliminado esta legislatura el programa de financiación al audiovisual

y la de financiación de contratos y lo han eliminado sin más sin sustituirlo por nada en plena crisis para arreglar esto el grupo socialista propuso

que se aprobó con los votos del pnv entre otros y sin embargo el gobierno lleva dos años sin aplicarla

la cuarta parte desde la pasada legislatura y sin embargo

ha bajado a más de la mitad el cincuenta y dos por ciento y en este contexto

a la tramitación de esta proposición de ley olvidando que sin producción independiente

nuevos actores ni técnicos ni directores ni ningún profesional nuevo y sin reconocer el valor estratégico de la afición propia como generadora de valores culturas y creadora de talento

los socialistas sí consideramos muy importante tener un sector cinematográfico y audiovisual vasco fuerte y por eso presentamos una proposición de ley

a su trabajo que ahora no recibe como decía por la descarga gratuita de sus producciones en cuanto al contenido de la ley decir que planteamos aprobar un impuesto a los operadores telefónicos no a los usuarios de veinticinco céntimos al mes por cada contrato de telefonía

creemos que es una cuestión de justicia no de tratamiento especial a un sector no planteamos en ningún caso utilizar impuestos finalistas

porque las descargas gratuitas les impiden cobrar algo razonable por lo que han tenido que invertir para crear y producir las películas en definitiva pretendemos que sean las empresas de telefonía las que paguen una pequeñísima parte de sus beneficios por las conexiones y de datos móviles para con ese dinero financiar la producción audiovisual sin que puedan repercutirlo a sus clientes además

muchos creen que ni existen y es la facultad de que el parlamento establezca

y el gobierno los ejecute esta facultad es un instrumento político de primer nivel que permite al gobierno ejecutar una política fiscal idéntica a los tres territorios dando un tratamiento a los fondos que se obtengan pero no se usa en cuanto a los fondos que se obtuvieran que vista la experiencia catalana serían del orden de siete millónes de euros servirían

cinematográfica y audiovisual de euskadi sin embargo el gobierno ha decidido rechazar la tramitación de esta proposición de ley y es legítimo sería legítimo si tuviera razones fundadas para hacerlo pero sorprende

de tan baja calidad técnica y tan agresivo en su expresión da la impresión de que el gobierno ha pretendido compensar su debilidad argumental

y cito textualmente es insólito y único en la política fiscal de nuestro país

porque en dos mil seis gobernando el lehendakari ibarretxe este parlamento aprobó el impuesto del agua con los votos del pnv cómo puede decir entonces el gobierno

si lo gestiona ura la agencia del agua del propio gobierno y lo afirma por escrito al parlamento en un criterio aprobado en consejo de gobierno y como argumento de valor

parece increíble sino fuera verdad el gobierno nos ha enviado un escrito oficial

y los impuestos que el propio gobierno aplica refleja una insolvencia jurídica y de gestión de este gobierno muy preocupante y el tono de sus observaciones

que tiene que ver cómo la oposición tiene que cubrir su inoperancia legislativa otra cuestión es si somos competentes o no para este gravamen a los operadores telefónicos y el gobierno entiende que de esta proposición y cito también textualmente pudiera deducirse una probables inadecuación al reparto de competencias establecido en el artículo cuarenta y dosb del estatuto bueno pues resulta que ese artículo

que al hablar de los ingresos de la hacienda general del país vasco como estarán constituidos digo dice después de hablar de las diputaciones que tienen otro camino que los rendimientos de los impuestos propios de la comunidad autónoma que establezca el parlamento vasco de acuerdo con lo establecido en el artículo cincuenta y siete de

para no seguir formarán parte de los ingresos de la haciendo general del país vasco es decir que este parlamento tiene competencia para por ley

aquí estaría por ley para imponer impuestos para

por si alguien sale diciendo que esto es interpretable quiero recordar que

josé antonio ardanza referida al juego

supongo que esto no lo cuestionará nadie al menos de la bancada del pnv dice que el estatuto de autonomía del país vasco así como la ley de relaciones entre las instituciones de la comunidad autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos el decreto legislativo por el que se aprueban la disposiciones legales sobre principios ordenadores de la hacienda general del país vasco conceden es decir todo nuestro entramado jurídico todo y lo dice una ley

a la hacienda general de la comunidad autónoma del país vasco el poder de establecer sus propios impuestos siempre que no recaigan sobre hechos imponibles gravados por el estado

bien cómo es posible que el gobierno diga que puede que no se esté cumpliendo con esta proposición de ley

nuestra ordenación jurídica lo que digo me he contenido en la expresión pero he querido que se me entienda muy bien

criterio el gobierno a este parlamento

competentes que no se vulnera nada pero en el fondo esto es mucho más grave con su apreciación el gobierno está renunciando a una competencia que le da el estatuto y que ya hemos ejercido así si en el futuro quisiera implantar otro impuesto

a los socialistas nos parece esto gravísimo es una contradicción absoluta de este gobierno que reclame competencias y a la vez renuncie a las que tiene sobre todo en algo tan importante como aprobar impuestos

a los operadores impide sumar su recaudación a la caja común para que se distribuya en el presupuesto claro

porque ha de servir para compensar al sector por el uso de los contenidos audiovisuales que al ser utilizados de forma gratuita no revierte al sector perjudicando gravemente su financiación y viabilidad como industria cultural

con el apoyo de todos los grupos excepto el del partido popular que se abstuvo

la siguiente objeción del gobierno es que esta medida no responde al modelo fiscal vasco pero cómo no se va a adecuar a nuestra fiscalidad

de leer todas nuestras leyes referentes al ordenamiento hacendístico y otro impuesto finalista el del agua

lo ha aprobado el parlamento vasco es que el parlamento lo aprobó sin ser competente es que todo eso no es nuestro ordenamiento jurídico hacendístico en fin

simplemente parece el desahogo de un cabreo que no tiene justificación les invito a que lo lean pero en vez de enfadarse este gobierno debería hacer leyes para resolver problemas

que las leyes las propone la oposición miren los productores vascos hablaron hace más de dos años con el departamento de cultura que dijo que le parecía bien

siguen sin hacer nada si habían decidido no aplicar esta medida al menos podían haber buscado otra para ayudar al sector que es lo principal lo que interesa pero

al no actuar el gobierno las dos asociaciones vascas de productores

luego se aprobó en cataluña lo mismo prácticamente por unanimidad como decía y finalmente los socialistas

porque el sector no aguanta más solo terminar manifestando el respeto por la decisión que adopten los grupos que luego comentaré pero sí en fin anunciar que quien esté de acuerdo con la ayuda al sector y que la fiscalidad puede hacerlo

siempre con un texto y luego en la tramitación mediante enmiendas se pueden modificar si hay algún aspecto que lógicamente deba ser mejorable o que

más que decirle exigirle que defienda el estatuto que no niegue

eso para empezar y para acabar a este gobierno que defienda el

muchas gracias señora presidenta nosotros evidentemente

esta propuesta de creación de este impuesto por múltiples motivos pero le diré que tampoco estoy de acuerdo con la exposición inicial que he hecho hoy

en fin para compensar la piratería que existe es que para compensar la piratería

hizo un gobierno socialista el que lo hizo se hizo el canon digital

solo en algunas fotocopiadoras supone más de doscientos euros por cada fotocopiadora por no hablar de todos los soportes de todo tipo que se paga el canon digital

la piratería se compensaba con eso y de hecho las sociedades de autores pues en fin mucho dinero han recaudado con eso

pero yendo directamente al texto que ustedes nos han presentado que se llama impuesto sobre la provisión de contenidos

de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas bueno pues le tenemos que decir que ya existe

este parlamento tiene competencia para crear nuevos impuestos siempre y cuando

y está gravado a los supuestos operadores además como sujetos pasivos del impuesto y está gravado por otro gobierno socialista por el del señor rodríguez zapatero en varias leyes

un par de años se publicó un informe de

en el sector de las comunicaciones por qué en españa el precio de la conexión a internet es más caro que en el resto de europa

no es tan ancha como en el resto de europa y sorprendentemente llegaron a la conclusión de que en españa se soporta una carga tributaria hace dos años del tres coma cuatro en el reino unido del cero coma siete y en alemania del cero coma cuatro y ustedes nos vienen a proponer aquí ahora que incrementemos un poquito más esa carga por la conexión a internet de todos los que estamos aquí incluido el parlamento este parlamento y los parlamentarios

pagar este canon porque supuestamente nos dedicamos a bajarnos películas piratas de la red y entonces hay que compensar

le diré que la ley catalana que usted ha fusilado y nos ha traído aquí se aprobó con el voto en contra del informe del propio consejo de trabajo económico y social de cataluña

de devolución y votó en contra de la toma en consideración de ese proyecto de ley y este impuesto

la conexión a internet de personas privadas y de empresas

de hecho cuando le decía

últimamente curiosa a la hora de inventarse digo al mes se inventan dos impuestos nuevos no sé si eso se le llama innovación o se le llama falta de dinero y de donde sea hay que sacar dinero y como sea

la ley catalana dice que el sujeto pasivo no son las empresas sino que son los ciudadanos digo las empresas de telecomunicaciones sino los ciudadanos porque esa ley estatal suya ya dice que los sujetos pasivos son las empresas de telecomunicaciones

el sujeto pasivo y usted hace lo mismo nos dice que somos nosotros los ciudadanos y las empresas privadas que se dedican o que tienen

y así piensan que esto de la doble imposición pues nos lo saltamos porque ahora lo pagan otros pero luego resulta que no es cierto porque ustedes para seguir haciendo usted copia una trampa catalana que bueno ellos verán ya está anunciado el recurso

del gobierno central y de todo el mundo y quiero decirle que se aprobó en diciembre del año pasado y la recaudación a día de hoy es cero y creo que va a seguir siendo cero durante mucho tiempo usted sabe y yo sé y todos sabemos que el canon digital cualquier impuesto que grava

sino el coste de la empresa lo pagamos los ciudadanos y ustedes no plantean un impuesto que grave o un impuesto que a determinadas

a estas empresas no ustedes plantean un impuesto que va a la cuenta de explotación como un gasto más de las empresas y que evidentemente como gasto más de esas empresas se compensa con los ingresos de esas empresas porque evidentemente tienen que tener beneficios porque sino

supongo que nadie estamos de acuerdo con eso por lo tanto al final lo íbamos a pagar también nosotros aunque ustedes digan que el sujeto pasivo es el ciudadano pero no el obligado a pagar es la empresa la empresa no va a pagar nunca cuando usted le mete un gasto más en la cuenta de explotación

audiovisuales a estas empresas la ley de financiación de radio televisiones las dos del partido socialista de rodríguez zapatero una del dos mil nueve y otra del dos mil diez

de los ingresos a las mismas empresas y con el mismo fin que se nos propone hoy aquí fomento del sector audiovisual

por otro lado tengo que reconocerle que además ya ha conseguido un éxito porque ayer

ya pueden acogerse a las ayudas del sector audiovisual

antes que otras veces para este año es decir ese éxito ya lo tiene usted hoy reconocido por el propio gobierno

específicas del propio departamento del gobierno vasco pero es que además como todas las empresas de este país

las ayudas y programas de todo tipo que tiene el gobierno que tienen las diputaciones y que tienen los ayuntamientos yo no voy a negarle a usted que es un sector muy importante pero al menos tan importante como todos los demás y nadie plantea crear impuestos específicos para financiar sectores

específicos y menos a costa de que los ciudadanos en general todos paguemos una carga aunque no lo usemos

los ciudadanos tenemos que pagar otra vez lo mismo por lo mismo

a las leyes que le he citado y esta nueva novedad autonómica

no he visto que su partido en ninguna comunidad de españa haya planteado este impuesto

en ninguna ni en las que han estado gobernando en la legislatura pasada ni he visto que figure en su programa absolutamente nada y yo en definitiva pues por todos estos motivos incluido en el de que tendríamos capacidad sí

la característica de los impuestos finalistas es la modificación de conductas o la internalización del coste que comportan no se entiende en este sentido un impuesto que sin coadyuvar a una política completa y ordenada por el legislativo a través de regulaciones generales

y lejos de finalidades públicas generales a conseguir en un sector determinado

las consignaciones presupuestarias se establecen en función de las prioridades presupuestarias vulnerar este principio terminaría por causar insolidaridad en el caso que nos ocupa el sector favorecido presenta las mismas condiciones de dificultad financiera que otros sectores sin ingresos afectados y en la propuesta

es una opinión consistente en un enriquecimiento gratuito a costa de los creadores de contenidos nos parece a todas luces insuficiente para justificar la afección finalista es indudable

si bien dentro del marco de la lógica es decir como una comunidad autónoma de régimen común

tanto desde el punto de vista recaudatorio como del hecho imponible objeto no voy a repetir lo que ya se ha dicho debe ser de manera ajena al concierto económico y en ninguno de los dos aspectos que acabo de apuntar se encuentra plenamente justificado que estemos ante un impuesto lofca al contrario se puede afirmar que tal y como está planteado

por lo tanto el gobierno vasco no renuncia a ninguna competencia como ha dicho el señor reyes y sí

el sistema fiscal vasco por lo tanto no estoy interpretando el artículo que usted decía del estatuto sino que le estoy diciendo que cómo interpreto

que no la justifica por otro lado no existe un análisis de coste beneficio y a nuestro entender y teniendo en cuenta que modifica la estructura impositiva general de euskadi genera una serie de riesgos inasumibles ante una propuesta tan tomada por los hilos

la dualidad sectorial y tributaria que se plantea pudiera tener una mayor lógica si primero diseñase una política pública

que en absoluto tiene porqué ser a través de ingresos finalistas en el caso que nos ocupa usted lo hace al contrario al revés en cuanto a la creación de varios fondos de marcado carácter sectorial

tanto de carácter sustantivo como presupuestario lo contrario es inseguro incompleto y negativo tanto para el sector como para los sujetos pasivos del impuesto

finalmente decir que el impuesto aprobado sobre esta materia en cataluña la ley quince barra dos mil catorce tiene un contencioso abierto con el estado en relación a la competencia para su dictado y aserción

en la iniciativa catalana se trata de garantizar parte de la necesaria financiación al modelo audiovisual catalán que se establece por ley

a diferencia de la proposición que debatimos que no se inscribe ni en una política fiscal general ni en políticas sectorial y sustantiva alguna

considera según manifestaciones del comisario de economía digital que el impuesto sobre adsl de cataluña para financiar el sector audiovisual

y la competitividad de las empresas de telecomunicaciones y traducirse en precios más altos para los clientes bien

a tratar de contestar algunas de las manifestaciones que usted ha hecho

bien al señor

el tono que ha utilizado que se corresponde yo creo con el mío que he sido

pero la argumentación me parece que ha sido muy digna no obstante

indica algo con claridad cuando hay un gobierno y un grupo que lo sostiene y viene un criterio del gobierno formal aprobado en consejo de gobierno a esta cámara y el grupo que lo sostiene

eso indica que no es de mucho valor que el propio grupo luego lo ha revisado lo ha analizado y ve que no tiene

aquello que yo he criticado en la anterior intervención esto me parece fundamental en lo que nos toca porque si el criterio del gobierno no fuera desfavorable ustedes a lo mejor hablaban con mi grupo hablaban conmigo y podíamos ver cómo

de la proposición de ley en el parlamento para como se hace siempre acordar o no matizar cuestiones porque esa es la cuestión se está negando sin argumentos

que se cae jurídicamente en cuanto a las apreciaciones que tiene es infumable y se está negando la tramitación de algo que durante el curso de esa tramitación se podía matizar el carácter finalista esto lo digo a todos los grupos es decir el carácter

es decir lo que es un trámite parlamentario por qué razón si es verdad que el sector lo demanda si es algo concreto si hay precedente de impuestos finalistas en la comunidad

yo creo que es más que el gobierno ha reaccionado de una forma visceral a una propuesta

que el sector las asociaciones del sector llevaban dos años tratando con ellos

apoyado por todo el sector por las asociaciones de todos los colores

simplemente emite un criterio para rechazarlo sin más con argumentos que no son de recibo y uno de ellos como le decía porque ataca

a la competencia de ese gobierno y niega lo que dice el estatuto y eso es muy serio y desconoce los impuestos aprobados en esta comunidad en épocas de gobierno del pnv con mayoría parlamentaria firmados por el lehendakaris

nacionalistas es muy serio y eso es lo principal me parece que estamos viendo aquí luego dicen ustedes que

audiovisual vasca tiene los mismos problemas que el resto de la industria no claro hay crisis les afecta a todos

al gobierno del partido popular a la insensibilidad del partido cultural perdón cultural no lo siento

en fin pero es que además tiene un problema que no es una observación personal gratuita es un hecho constatable en todos los foros en que se trata este tema

son un factor añadido que a un sector como el audiovisual vasco atomizado pequeño

aun más y le tiene contra las cuerdas y eso significa la producción cultural vasca y significa todos los trabajadores que no solo los que han perdido el trabajo sino los que están trabajando en precario por esa situación y dicen ustedes

que la administración acudirá es decir que de alguna forma seguirá apoyando

a este sector el señor damborenea en fin

ha dicho que ha salido una orden ayer que garantiza la financiación esa orden sale todos los años solo solo que una cuestión

ha salido con uno coma ocho millónes y estamos hablando que no sé

esa orden salía con más de tres millónes no estamos hablando de que la administración no saque convocatorias subvencionales mírese los papeles estamos hablando

a un sector que está padeciendo y no tiene capacidad de respuesta y que además está golpeado por otros asuntos de eso estamos hablando y por eso el interés en este momento para

podía matizarse ese asunto en la tramitación parlamentaria pero no se ha querido porque simplemente se quiere negar la tramitación hay un asunto el de la doble imposición que ha aparecido también

que el gobierno de españa haya interpuesto un recurso no es cierto hay una comisión constituida

y el gobierno de españa que están tratando el asunto y luego lo llevará la inconstitucional o no luego lo llevará o no y cuando lo lleve veremos a ver qué pasa porque

o el iae puede suponer porque ya existen una doble imposición hombre es un brindis al sol porque es que eso entonces es doble imposición para todo porque el iva afecta prácticamente a todo me parece que son

de recurrir más que otra cosa pero respecto a lo que dicen de que ya hay el sujeto imponible ya está grabado por ejemplo

las televisiones que operan un cinco

privadas o públicas a la producción cinematográfica europea

ustedes saben que eso no es un impuesto un impuesto es cuando hacienda graba algo establecido por una ley para dedicarlo a otra cosa pero es que eso no es lo que ocurre es que cuando etb con telecinco producen al amparo de ese dinero

no están regalando ese dinero no lo están perdiendo están en este caso por ejemplo obteniendo un beneficio enorme o cuando compran los derechos de emisión

con esos derechos de emisión emiten películas europeas que la publicidad

es para ellos dónde está la doble imposición si no es un impuesto es un beneficio es una inversión solo que obligada qué pasa con el cero coma nueve por ciento que han dicho

los operadores a radio televisión española pues hombre yo

como argumento es que lo hacen porque televisión española decidió quitar la publicidad y como eso es un beneficio para el resto de agentes

a aumentar sus ingresos publicitarios entonces destinan obligatoriamente un cero coma nueve por ciento para compensar esa pérdida de televisión pero eso no es un impuesto ni mucho menos es el hecho imponible

no hay ningún hecho imponible igual y permítame decir oiga pues si otros no lo hacen

yo propongo hacerlo con argumentos por la necesidad del sector vasco que ellos quieren y se puede razonar y está dispuesto

pero con argumentos sin aquilatar y bastante generales simplemente lo que se quiere es que esto no vaya para adelante

que me importa con un criterio del gobierno infumable bien alguna cosa más me queda

réplica para seguir aclarando las cosas que se pueden decir simplemente añadir que a mí al grupo socialista tampoco nos gusta los impuestos finalistas con carácter general claro

establecer a partir de esos ingresos un gasto de acuerdo con las políticas generales y cada año y en el parlamento a propuesta del gobierno claro

estamos hablando de una cuestión excepcional por un motivo concreto muy justificado para un sector vasco muy débil y que se puede hacer

señor arieta araunabeña en la doctrina que me he preocupado de mirar bastante los impuestos finalistas

pueden ser para cualquier cosa que repare una situación que se entienda que debe ser reparada

y eso si lo aprueba el parlamento ahí va luego uno puede entender

pero que se puede eso seguro no hay ninguna contraindicación

en esta proposición de ley se obliga a que sean los que suministran los servicios de adsl de telefonía móvil quienes paguen los veinticinco céntimos

imponer no tienen por qué ir al consumidor porque hay una autoridad vasca de la competencia a la que se puede

sí termino presidenta a la que se puede recurrir lógicamente y que tiene que estar

que unos contratos que son específicamente de euskadi para personas físicas o jurídicas radicadas en euskadi

en extremadura o en madrid por el mismo contrato por operadoras de ámbito general como telefónica como ono no lo veo yo tan claro

señor reyes yo cuando le he hablado de doble imposición no le he hablado ni del iva ni del iae

tal le he hablado del canon digital le he hablado

y le he hablado de la ley de financiación de la corporación de radio televisión española que en su artículo cinco le voy a leer un poco rápido lo que pone aportación a realizar

calculadas sobre sus ingresos brutos lo mismo que plantea usted aquí

los mismos que usted dice aquí que son los obligados pero que no que no somos los ciudadanos porque el sujeto el sujeto pasivo sí son estos en su propuestas somos nosotros sí por qué servicio telefónico fijo servicio telefónico móvil proveedor de acceso a internet lo mismo sí sí el mismo hecho el mismo hecho

uno ya está gravado el sujeto pasivo son los que usted dice aquí que son los que tienen que ser pero no porque si no sería lo mismo sería tan literal que claro es que no tendría un pase

yo le digo lo que yo he entendido al leer aquí literalmente lo que pone y cuando veo que los obligados al pago son los mismos que el hecho imponible es el mismo y que

ciento oiga qué quiere que le diga pues verde y en botella los catalanes tampoco se han en fin esta vez la innovación tampoco ha llegado

en el trámite de enmiendas las podemos arreglar oiga en el trámite de enmiendas yo no me puedo inventar un hecho imponible en un impuesto o sea yo podré

es sobre otras partes del impuesto si se sube más si se pone menos

el hecho que se grava en el impuesto y quién es el sujeto pasivo

un hecho imponible ni para este sector ni para ningún sector luego nos habla

jamás en ningún año de la historia de españa ni del país vasco ni de cataluña ni de ningún sitio

ni se han vendido tantas entradas en los cines ni tantas entradas en los teatros porque ese iva lo pagamos los ciudadanos no lo pagan ellos vale bueno pues nunca

hemos ido tanto al teatro por lo tanto oiga qué quiere que le diga

el que grava el sector automovilístico claro no por qué un sector

tiene que tener un iva distinto de otro sector industrial por qué alguien tendría que dar alguna explicación

alguien tendría que dar una explicación lo cual no quiere decir que yo esté a favor de no bajar ese impuesto

a ver si usted me entiende a todos por qué porque estoy seguro de que van a ser más rentables las empresas y van a vender más porque se rebaja el precio del producto pero de todos los productos de todas las empresas

suya no del gobierno y eso yo porque no estoy de acuerdo como le he dicho

ni en el argumento ni en la forma y desde luego no estoy yo aquí para inventarme un sujeto pasivo vía enmiendas en el trámite posterior ni un hecho imponible nuevo para inventarnos un impuesto yo lo que le quiero decir es que

puestos a mirar creo que este sector que usted dice que está tan desfavorecido

además de acogerse a todas las ayudas de todos los departamentos de todo el gobierno

a la producción de ningún otro sector industrial en este país

que gracias a su iniciativa la orden con las ayudas para el sector ya se ha publicado he dicho que antes que otras veces que es menor que usted quiere que sea mayor le hago una propuesta cuando vengan el presupuesto del gobierno vasco haga una enmienda

eskerrik asko señor reyes no ha rebatido mi argumento y mis argumentos han sido contrarios a la toma en consideración

no he defendido el criterio del gobierno y no me ha respondido

en cuanto a lo de defender el criterio del gobierno o no lo que yo le he hecho es una lectura correcta del criterio del gobierno sobre una interpretación incorrecta que considero que ha hecho usted así de claro sin más o sea que claro que le he defendido

pero desde una lectura correcta del mismo no como lo ha hecho usted la verdad es que aunque el debate sobre la idoneidad de la propuesta que usted ha hecho

insisto que considero que no ha rebatido los argumentos claves que le he dado

sí voy a decir sobre lo que está haciendo el gobierno vasco en coherencia con las consideraciones que he hecho precisamente al comienzo de mi primera intervención

está trabajando en varias direcciones haciendo un análisis integrado del sector de los cambios que se están produciendo en el mismo besteak beste

ardatzak darabilen lanean por lo tanto señor reyes

ninguna otra salida que lo que usted plantea creo que es equivocado por su parte y además que estamos ante una cuestión que realmente necesitaría

cosa que no lo tiene y creo que usted en este caso ha equivocado el planteamiento eskerrik asko eskerrik asko

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señora consejera

finalmente a favor de la toma en consideración porque lo que el grupo socialista nos ha propuesto no está suficientemente argumentado

argumentos de peso como para poder votar a favor de la toma en consideración y estudiar después la posible presentación de enmiendas parciales lo que se propone consideramos que no puede corregirse después con enmiendas parciales y consideramos también que cuando se propone una proposición de ley el proponente lo que tiene que intentar hacer es

no ha conseguido ese objetivo podemos compartir la preocupación del grupo socialista por la situación en la que se encuentra el sector audiovisual pero

lo suficientemente serio como para aceptarlo sin que se presenten argumentos de peso

de que el gobierno vasco tenga competencias para ello de hecho pensamos que no es la vía correcta

ya existen otras por no decir que otros sectores también se encuentran en dificultades o que incluso se encuentran en peor situación que el sector audiovisual a pesar de que el grupo socialista afirma que es una necesidad preventoria la creación del impuesto sobre la producción de contenidos

y que además tal cosa no afectará en ningún caso al consumidor consideramos que no está suficientemente explicado ni argumentado ni una cosa ni la otra de hecho más bien parece obvio que ese impuesto lo terminaríamos pagando los ciudadanos tal como señala el gobierno vasco

que se nos ha presentado generaría una situación anómala que beneficiaría supuestamente a un solo sector a través de un impuesto finalista algo que sería

aislada de lapolítica fiscal general vasca la cual por cierto debería ser única

analizada la propuesta socialista carecemos de argumentos sólidos para apoyarla nos urgen reparos insuperables y nos invaden dudas insalvables que se haya hecho en cataluña o que el sector atraviese dificultades son argumentos escasos

votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta y que se pueda hacer que se pueda implantar este impuesto no quiere decir quesea conveniente hacerlo de hecho

esta propuesta presentada por el grupo socialista parece que está destinada a conseguir unos cuantos votos en definitiva el grupo socialista no ha sido capaz de convencernos y más allá de que no compartamos todos los argumentos planteados por el gobierno

nos parecen que estos tienen un mayor peso por todo ello en fin no hemos votado a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y nos hemos abstenido gracias

muchas gracias presidenta señoras y señores parlamentarios

consejera buenos días bueno después de la interpelación que mantuvimos el pasado pleno

esta moción anunciada también en el mismo hace catorce años

para la pelota vasca cuarenta y dos se describían en aquel momento acciones lo conformaban de cara como decía el propio texto a situar a la pelota vasca en el ámbito cotidiano de la sociedad tanto en el plano educativo

en el empresarial también se vio la necesidad de definir el propio producto

y el mercado en el que se encontraba se hablaba de muchas cuestiones objetivos mejorar el modelo de gestión

la propia gestión del deporte el cambio cultural que exigía

de la mujer también otros también objetivos tuvo un procedimiento de definición a través de la marca pelota

de ese plan tuvo un desarrollo presupuestario tuvo una serie de acuerdos y de convenios con la federación vasca de pelota consejo mundial de pelota con la confederación de ikastolas

desde nuestro punto de vista claramente debió de haber sido ampliado o

aquel tuvo una buena voluntad pero fue manifiestamente mejorable y resultó insuficiente y con poco

a los hechos y al momento actual nos tenemos que remitir como decía en la interpelación que tuvimos el pasado pleno la ley del deporte del país vasco

su disposición adicional quinta que con el fin de impulsar otros deportes también característicos y autóctonos pero la pelota vasca el gobierno vasco aprobará en el plazo de un año en aquel momento en mil novecientos noventa y ocho se hablaba de aprobar ese plan en el que intervendrán las federaciones el consejo vasco del deporte y

con la disciplina y con la pelota vasca hablaba de objetivos

para la consecución de dichos objetivos responsabilidades de las diferentes entidades públicas y privadas en orden a la ejecución de esas medidas plazos procedimiento

revisión del plan promoción exterior etcétera en definitiva luego llegó también en ejecución de esa ley

se elaboró después a partir de entonces el plan estratégico de la pelota vasca dos mil seis dos mil diez vuelvo a decir la ley

disposición adicional pero hasta el dos mil seis no se aprobó

de actuación que en materia de la pelota vasca correspondía realizar a los agentes implicado

aquello fue en aquel entonces pero efectivamente hubo un plan estratégico que todos tuvimos la oportunidad

dicho antes que fue insuficiente y que fue corto y efectivamente es así porque el tiempo lo ha demostrado y la situación pero en cualquier caso ahí estuvo y

de referencia también como he dicho antes la federación de pelota vasca de euskadi el consejo mundial de la pelota vasca de ikastolas también eran agentes llamados a desarrollar acciones contempladas en el plan

planteados y definidos negro sobre blanco los presupuestos del gobierno vasco de aquella

que estamos abordando una cuestión menor pero yo creo que tiene entidad suficiente además después

también después de una reciente comparecencia de responsables federativos

donde se puso de manifiesto entre otras cuestiones que se abordarán en el momento oportuno

dijimos en la interpelación ahí se tocaron muchos temas pero algunas tendrán un momento parlamentario distinto y se vio la necesidad

estratégico ante lo que es el definitivo ante la consideración y eso lo decían los

más ligados íntimamente a la práctica deportiva

ante la consideración de la situación crítica que vive la pelota vasca en sus distintas modalidades ellos ponían el acento en algunas en la cesta punta

en la pala pero bueno en cualquier caso ya hablaban en términos generales en relación con la pelota vasca de

en sus distintas modalidades y lógicamente eso tuvo que hacer reaccionar de alguna manera no efectivamente

o institucionales o empresariales que van a comparecer pero en cualquier caso yo creo que era bueno

también los responsables federativos hablaban

ellos que vinieron a esa comparecencia y otros con los que hemos podido

hablaban de la necesidad de lograr un diagnóstico certero

situación actual y ahí está una de las claves un diagnóstico certero de la situación actual en la que tenían que participar también y lo reclamaban todos los agentes implicados como decía yo el otro día

algunas acusaciones realizadas hay comparecencias pendientes del presidente del consejo mundial de pelota del director de deportes del gobierno vasco

es la que nos debe ocupar de una manera además constructiva porque yo creo que estamos en sintonía después de lo que también se tramitó y las respuestas de la señora consejera yo creo

además en el momento político que estamos ahora constitución también de las nuevas diputaciones

abordar de una manera inmediata esta cuestión y he hecho referencia

ese plan estratégico pelota dos mil seis dos mil diez después hay otros documentos el documento

pelota vasca deporte olímpico incluso esos planteamientos tan interesantes estaban sobre la mesa y están y también el gobierno anterior desde luego

tuvimos la oportunidad de hablar de estas cuestiones de una manera pues constructiva y viendo y enfocándolas también estos otros documentos el congreso mundial de la federación internacional de pelota vasca me parece que fue en guadalajara en julio de dos mil once y sus conclusiones en un documento que se llama frontón

que es donde también hablaba de cuestiones y claves en relación con el redimensionamiento de las modalidades

también han existidos iniciativas puntuales como el foro de gernika abordando la cuestión de la

todos los días a pie de obra no de las respectivas federaciones implicadas

también es relevante y lo decía antes en el momento en el que estamos ya que las diputaciones que se formarán en breve también han de participar

que tienen y porque lógicamente es bueno que efectivamente el gobierno vasco juntamente con el entramado federativo las empresas los clubes y las diputaciones

más colateral seguramente pero coadyuven a la realización

esta moción ya hacíamos un análisis el otro día también del momento complicado económico o en lo público los fondos presupuestarios en materia de deporte han descendido de una manera importante en los últimos tiempos

si puede haber más disponibilidad vamos a entender y estudiar compromisos de futuro porque en este tema de la pelota vasca además si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie así que vamos a hacerlo yo creo que es lo fundamental

el que mejor lo identifica seguramente de una manera más contundente y otra cosa y muy importante casi imprescindible

va a ser para la pelota vasca un ámbito de encuentro un ámbito de acuerdo

muchos desencuentros hemos sido testigos de los mismos además de promocionar el propio

va a ser un ámbito de encuentro porque el entramada federativo se mueve en un momento de

y yo creo que un documento que va a ser estratégico que va a ser ejecutivo pero también va a propiciar la reflexión puede hacer que eso sea así además es que se van a hablar de cosas en ese documento importantes

mucho más innovador que el documento dos mil seis dos mil diez en relación con la redimensión de las modalidades en relación con

federativa del papel de los clubes o de otro tipo de agentes implicados

la moción con dos apartados con dos párrafos el primero que el parlamento vasco

a través de un proceso innovador el deporte de la pelota vasca en los próximos cuatro años los próximos cuatro años tiene que haber un documento estratégico que hable de plazos luego

y habrá que hacerlo también estratégicamente pero bueno en cualquier caso yo creo que a la hora de hablar de organización de presupuestos de modernización de educación de investigación de participación

nosotros decíamos que se insta al departamento de educación cultura y política lingüística del gobierno

de su dirección de deportes y juventud lidere lidere vamos a ver

de coordinar de aunar criterios de tener una batuta de armonización y de equilibrio más que

y que integre en ese proceso de elaboración a las instituciones con competencias en materia deportiva pues vamos a entender fundamentales las diputaciones aquí en este tema pero bueno

que decir algo y que lo van a tener que decir sobre todo en la organización de los eventos deportivos como todos conocemos

también además de las instituciones a los clubes a las empresas deportivas sabemos el peso

en estas cuestiones y fundamentalmente al

y de su aportación su pacificación y su anuencia y desde luego engrasar algunas relaciones y dar más confianza eso va a ser importante también

nos hemos centrado nosotros y recogiendo un poco el sentir también de algunas cuestiones que se nos han planteado yo agradezco al grupo socialista la enmienda constructiva la señora rojo ha presentado una enmienda constructiva y yo creo que la compartimos plenamente pero creo que lo que ella planteado el texto original de eso de ese concierto de esa colaboración federación clubes ayuntamientos y diputaciones trata ese plan estratégico y yo le agradezco su enmienda pero en cualquier caso yo creo que

efectivamente hemos retirado la enmienda que habíamos presentado porque entendemos que el resto de grupos apoyará la iniciativa original del señor barrio y en pro del acuerdo desde luego pues hemos decidido retirarla efectivamente este tema

en el que tratamos el tema de deporte y efectivamente hay un problema interno que desde luego

por tanto entendemos que el plan es necesario es necesario hacer un diagnóstico que puedo compartir el que ha hecho el señor barrio pero creo que el gobierno vasco debe trabajar con las instituciones implicadas

este tema y empezar a trabajar por un deporte que efectivamente no pasa su mejor momento necesita un apoyo que quizás otros deportes pues no lo necesiten de una forma tan fuerte como

lo que sí queremos recalcar desde el grupo socialista es la necesidad de que para el plan estratégico para el diagnóstico para las soluciones se tengan en cuenta las instituciones implicadas y también los

y desde luego que el gobierno vasco haga lo que esté en sus manos para intentar solventar esa situación interna que desde luego está pasando factura al deporte y que no hace

de un posible empuje a este deporte que desde luego consideramos que lo necesitan

para escuchar la otra versión de esta situación interna que parece que existe y a partir de ahí

políticos trabajaremos en lo que esté en nuestras manos para intentar solucionar el problema nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

puesto que en el dos mil seis el plan estratégico se creó con el propósito de impulsar la pelota vasca con el mismo propósito de entonces este gobierno plantea hacer un nuevo plan estratégico a través de la dirección de deporte y juventud este gobierno

su intención de llevar a cabo un nuevo plan estratégico dicha noticia ha tenido muy buena acogida por ambas partes hau da legebiltzar honetan sailburuak esan ziguna

brevísimamente con su permiso desde el escaño para agradecer a todos los grupos parlamentarios el haber asumido esta moción efectivamente como ha dicho el señor iparragirre había una buena sintonía en el trámite

interpelación pero yo creo que es bueno que por parte del parlamento vasco exista el compromiso y la fuerza del acuerdo que va a existir hoy un mayor compromiso y desde luego una mayor vinculación

va a tener que cumplir y en ese sentido se lo agradecemos también esa disposición yo también me sumo a las palabras de la señora ubera en relación con el aplauso a tanta gente que anónimamente que de una manera voluntaria

por la pelota a tantos federativos aficionados a tantos voluntarios a tantos

que ha tenido que trabajar en ese sentido y efectivamente discriminación positiva discriminación positiva eso es lo que es un plan estratégico eso es lo que es un plan estratégico

y fundamentado en el acuerdo mucho mejor además yo lo decía en la primera parte de la intervención si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie

proceso innovador de modernización de redimensión de reflexión pero lo que tiene que haber ahora también es mucho cariño muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

europako parlamentuan bertan izan zen mobilizazio soziala horren adibide porque lo que ayer se dio en el parlamento europeo no es más que el esperpento por nerviosismo

en buena medida tendrá que ver con la movilización social y con el temor

y las eurodiputadas a verse retratados de una forma que cada vez disgusta a más población europea pero la cronología era la siguiente ayer o en esta semana se tenía que votar en el parlamento europeo se tenía que debatir y votar en el parlamento europeo la posición

finalizada la novena ronda de conversaciones y antes de empezar la décima ronda de conversaciones iba a ser una votación no decisoria

que se quedara en una votación consultiva se presentaron enmiendas ante cuestiones que resultan cada vez más preocupantes para cada vez más ciudadanos y ciudadanas

y para eso se realizan diferentes enmiendas más de doscientos parece ser y con algunas aparentemente consensuadas entre las principales fuerzas de la eurocámara

tribunal de controversias estado inversor privado pudiera tener cabida dentro del aval

y finalmente deciden no realizar la votación por temor a perderla ante las discrepancias en uno de los grupos cuantitativamente más significativos de la propia cámara el de la autodenominada socialdemocracia europea pero aún así cuando ven que el debate o que la votación está en riesgo o no siendo vinculante deciden además ni siquiera pasarlo a debatir y lo consiguen con una victoria pírrica

que hoy refleja la prensa muy destacadas y notables esa es la secuencia de lo que pasó ayer y ese es el mejor ejemplo de lo que ha supuesto la opacidad y la falta de transparencia

y los estados unidos un proceso absolutamente opaco de espaldas a la ciudadanía y de los representantes de la ciudadanía europea los y las eurodiputadas no se nos ocurre mayor desprecio a la voluntad popular que lo que se está haciendo con este tratado y no se trata solo de una opinión particular no hay más que ver lo que en las últimas semanas ha aparecido en prensa en relación al acuerdo también comercial para la redefinición de los servicios públicos dentro del marco de aplicación entre la unión europea y los estados unidos y las filtraciones que ha hecho wikileaks sobre esto mismo resulta escandaloso

por su propio contenido por su sensible contenido a los ojos y a los oídos de la ciudadanía europea iba a ser secreto durante cinco años una vez fuera aprobado es

lo que nos estaban aplicando esa es la lectura que también parece

y por qué se da esa opacidad esa falta de transparencia absoluta y total

pues probablemente por el liderazgo evidente que ejercen las transnacionales y sus entidades

a la hora de dirigir el transcurso de las negociaciones probablemente copiando o emulando

de la política española pero también es

probablemente lo sepan ya todos ustedes cómo es el formato pero por si alguno o alguna no lo conoce señalar

durante dos horas y no más en un cuarto pequeño reducido con un funcionario se supone que de confianza no del eurodiputado sino de la comisión de negociación

esas son las condiciones de análisis y estudio que se imponen a los eurodiputados para poder

veo que alguien le parece poco relevante yo me pregunto en esta cámara en este parlamento en la actualidad

negociada y elaborada por las constructoras y que solo les dejaran a ustedes a los parlamentarios y parlamentarias que están elaborando la ley de vivienda dos horas

seguramente a todos y a todas nos parecería indignante nos parecería una ofensa y un insulto a la representación popular que ostentamos y por la que estamos aquí todos y todas pues eso

y el oscurantismo y el secretismo al que hago alusión no es ni siquiera una posición numantina de eh bildu o de las fuerzas que nos oponemos al ttip es que lo ha dicho señor garcía bercero el director o el

más transparencia y que se han producido defectos y lo señalan medios de comunicación que no son precisamente los más cercanos a euskal herria bildu hoy mismo el deia

negociado tan a hurtadillas que se desconoce todavía su posible alcance real el veinticinco de mayo el correo tampoco un medio a fin

señala en relación con esto y la periodista para tratar de arrojar algo de luz las reuniones de los equipos negociadores se caracterizan por su opacidad esa es

una lectura subjetiva de nuestra formación política y por eso presentamos esta iniciativa porque lo lógico es que desde aquí hagamos todo lo que está en nuestra mano para revertir ese oscurantismo esa opacidad cómo dando pasos en sentido contrario tan sencillo como eso es lo que proponemos hoy y aquí en esta cámara

izango gara hainbestetan adierazten dugunarekin porque esa es la virtualidad del texto que presentamos hoy de la proposición no de ley que presentamos hoy consultar a la ciudadanía informarla darle todas las oportunidades para que forme una opinión y a partir de ahí en su lectura crítica de las cosas o en sus capacidades cuál tiene que ser la posición que mantenga esta cámara que mantenga este gobierno en relación a este tratado y creo sinceramente que no hay pretextos ni excusas de largo alcance para no hacerlo no se puede que sería un proceso acelerado sin falta de tiempo las propias fuentes más inspiradas en la necesidad de aprobar este acuerdo nos hablan del dos mil diecisiete dos mil dieciocho como fecha posible de aprobación de finalización de las negociaciones entre estados unidos y la unión europea para la firma

para trabar una campaña de información de sensibilización de confrontación de opiniones y de impresiones y finalmente consultar a la ciudadanía ustedes tendrán la oportunidad de señalar las bondades que le confieren a dicho acuerdo y nosotros tendremos la oportunidad de denunciar las para nosotros y nosotras certeras amenazas que cierne sobre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que opine la ciudadanía

nos hemos lanzado a pedir el voto de los ciudadanos y les hemos dicho una cosa con claridad

para que fuera más sostenida más respetada por los y las ciudadanas y que lo fuera porque les tenía más en cuenta porque era capaz de detectar cuáles son sus necesidades y cuáles son

un ejercicio aquí para que eso sea real para que no quede solo en un cebo electoral con poca carne con poca carnaza pero sin ninguna voluntad práctica de llevarlo a cabo

de la comunidad autónoma vasca al igual que los de nafarroa ya nos preguntaron sobre qué nos parecía la incorporación a la otan cierto es que no nos hicieron ni caso

en hego euskal herria pero ya se consultó incluso con fechas mucho más recientes también se consulto sobre referéndum para la constitución europea

sugerencia se tendría la oportunidad de enmendar ese déficit democrático que supuso la votación en el congreso de los diputados en junio de dos mil catorce

que decidieron votar en contra de convocar un referéndum sobre el ttip en el conjunto del territorio del estado español pues si ellos no quieren hacerlo

que eran lo suficientemente buenas como para no tener que consultar a la ciudadanía porque iban a aplaudirlo no sé si con las orejas pero desde luego a rabiar

y de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de opinar sobre esta cuestión es tan sencillo como eso

donde ustedes como digo puedan vender las bondades que le confieren y nosotros señalar las amenazas que le otorgamos tan sencillo como eso y siendo conscientes

es en la práctica de mayor debilidad porque todavía hoy mayor la fortaleza de los poderes mediáticos de los lobbies de las entidades que apoyan el tratado que quienes nos manifestamos en contra

para aglutinar al conjunto de fuerzas que resistimos y que nos oponemos al tratado transatlántico de comercio e inversión al ttip tan sencillo como lo que acabo de decir y nosotros diremos

porque ya existen relaciones comerciales entre la unión europea y estados unidos

porque ya existe la posibilidad de que las empresas vascas o cualquiera interaccionen con las del otro continente y lo hacen con normalidad y a tenor de los resultado de exportación por los que nos suele

estamos planteando que este acuerdo trae mucho más malo que lo que de bueno puede traer para unos pocos

a tratados de última generación que esconcen un verdadero peligro porque arrinconan la democracia porque eliminan la democracia de sus normas de funcionamiento básico

y la cláusula trinquete que tiene un nombre gracioso probablemente lo que permite que se puedan seguir incorporando nuevos elementos al tratado votado por la ciudadanía o por los parlamentos nacionales si no es por la ciudadanía con carácter posterior a la firma del acuerdo

que acaba convirtiéndose en otra por la presión de las multinacionales y eso es un cheque en blanco para las multinacionales y esa es la perversidad de los tratados de última generación que también incorpora el ttip y que ya ha incorporado el nafta o el propio

también de la población vasca probablemente las multinacionales se mueven por intereses a nosotros y a nosotras nos exigen los ciudadanos que nos movamos en la defensa de las ideas

que garanticen y salvaguarden la dignidad del conjunto de las personas y diremos también que es una amenaza evidente para la privatización de servicios públicos para desmontar

a ocupar espacios que garantizábamos para los servicios públicos para garantizar mayores niveles

y sobre todo y fundamentalmente diremos que es un ataque frontal a la soberanía de los pueblos de los estados y de las naciones que supone dejar en manos de las multinacionales las decisiones más importantes que puedan tomar los pueblos y las naciones

de algo que también se está discutiendo en esta cámara en la actualidad en esta cámara se está debatiendo sobre el fracking y se está

si en torno a la paralización a la prohibición del fracking o a una moratoria

daría igual lo que aprobará este parlamento porque a través

podrían como ya se ha hecho en canadá con el fracking también

con la única exigencia de que tuvieran una oficina comercial abierta en cualquier otro lugar que no fuera el estado español por tanto a euskal herria le impondrían el fracking pese a que este parlamento y su ciudadanía dijeran que no al mismo esa es la realidad en la que nos movemos finalizo con una cuestión en un anterior debate se señalaba

sobre la posición que estaban teniendo y sobre lo que les dirían algunos si dijera lo que dice

algún partido aparte de eh bildu sostuviera como syriza que si por ellos fuera no se aprobaría

a partir del impulso de iniciativas legislativas populares cuestión que en breve veremos y votaremos en esta cámara

votando una proposición de ley que modifica y actualiza y mejora el actual texto al respecto u otras un trabajo loable la ciudadanía reclama más participación la administración debe proporcionarle instrumentos que eleven la calidad de nuestra democracia información transparencia

por eso se desarrollaron herramientas tales como el portal irekia gobierno abierto y otras

no cumple ni de lejos con los requisitos para ser aceptada para ser reconocida como uno de esos instrumentos

que hacen que los y las ciudadanas mejoren su conocimiento y participación democrática

se nos plantea una consulta sobre el acuerdo trasatlántico para el comercio y la inversión

digo negociando porque a día de hoy no se ha acordado ningún texto y por eso entre otras razones nos parece fuera de lugar la proposición cuando apenas se ha pronunciado el pasado veintiocho de mayo la comisión de comercio internacional del parlamento europeo sobre las recomendaciones a la comisión europea para que las tenga en cuenta en la negociación en curso no entendemos

para por conocer la opinión de los ciudadanos sobre un asunto que todavía no está cerrado al que le queda un largo recorrido antes de la toma de postura final

que una vez se ha alcanzado y si es así el acuerdo este debe ser ratificado por el propio parlamento europeo y por los veintiocho estados miembros de la unión europea nos sorprende pues

ciudadanía europea y por lo tanto a la vasca pero que puede ser percibida como mucho más lejana y complejas que otras a las que me voy a referir

durante el pasado mandato de los ayuntamientos muchos ciudadanos y ciudadanas solicitaron consultas sobre decisiones adoptadas por los equipos de gobierno de bildu en esos ayuntamientos acuerdos conocidos perfectamente por la gente con repercusión directísima sobre sus comportamientos

a las consultas solicitadas y que no se realizaron sobre la recogida de basura doméstica el llamado sistema puerta a puerta impedirlas fue la actitud de eh bildu

a la actitud que mantenían tantas personas vecinas de aquellos municipios qué incoherencia por su parte señor matute usted que se quiere vender aquí como el campeón de la participación y de la democracia real no hizo nada por escuchar a quienes querían hablar sobre cómo debería organizarse la recogida de la basura que generaban qué sentido tiene promover una consulta

que no está ni mucho menos cerrado y sin embargo impedirla sobre algo decidido y cercano cómo se puede exigir una consulta sobre una decisión que corresponde al ámbito importante

sobre decisiones que toma la institución más cercana como son los ayuntamientos no vamos a apoyar su propuesta de consulta por incoherente extemporánea y alejada de la realidad

el debate sobre los contenidos de un posible acuerdo en primer lugar

que permitan corregir los desajustes que aquella provoca hemos defendido y seguimos defendiendo el estado de bienestar producto de la redistribución de la riqueza operada desde el estado

en la economía de mercado del capitalismo de casino la crisis que provocó y las medidas de austeridad que la derecha ha adoptado solo para los más débiles está produciendo un receso un retroceso

a pesar de ello creemos que hay que seguir peleando en ese contexto de economía de mercado para poder controlar a los poderes desregularizados y lograr recuperar y avanzar en nuestro estado social

países que después de la caída del muro de berlín se

aunque sea paso a paso y lentamente lo están haciendo y el ejemplo más cercano es cuba por otra parte pensamos el comercio internacional y de esto trata el acuerdo al que nos estamos refiriendo es un estímulo para el crecimiento

y de esto es de lo que se trata como decía este acuerdo entre la unión europea y los estados unidos conocemos las dificultades y reticencias que suscita un acuerdo de este tipo no nos vamos a poner exquisitos sobre el mismo no vamos a levantar expectativas idealizadas sobre él no vamos a decir a nadie que va a suponer el remedio a nuestras penurias

apoyaremos cualquier acuerdo apoyamos eso sí la negociación de un acuerdo justo y equilibrado entre la unión europea y estados unidos los socialistas de momento

que se aprobaron en el dictamen de la comisión del veintiocho de mayo que intenta marcar a la comisión una línea de negociación que es su papel como he dicho antes una vez alcanzado el acuerdo

había un declarado interés de la derecha europea por no imponer ningún tipo de condiciones a estados unidos es decir dejar fluir las cosas en el terreno de liberalismo más incontrolado han sido precisamente los socialistas del parlamento europeo los que han trabajado y se han esforzado para que el dictamen incluyera

enmiendas por ellos presentadas enmiendas que fueron por cierto en muchos casos apoyadas por los grupos de izquierda unitaria y los verdes aunque estos no votaron lógicamente

garantizar la transparencia del proceso de negociación era y es una de las preocupaciones que manifestaron los socialistas conscientes

de que el hermetismo que ha guiado a la comisión ha sido un grave error y que ha creado

de esta manera se ha logrado que en el dictamen en su apartado e que consta de siete puntos se incorporen directrices

no dos horas como usted ha dicho eso es lo que había antes el dictamen dice que los

esta información deben garantizarse un amplio debate público y se debe alentar a los estados miembros a mantener informados a los diputados de sus respectivos parlamentos

de la comisión de comercio internacional del parlamento europeo

ha sido el relativo a los servicios aquí también los socialistas han conseguido que quede

por ejemplo los servicios públicos y señor matute se excluyen se excluyen en las directrices que le marca que quiere marcarle el parlamento a la comisión

vale y como digo el agua la sanidad los servicios sociales o la educación se excluyen

negociados o que pueden ser ofertados directamente por empresas mediante las enmiendas socialistas se han preservado los estándares europeos en materia de protección social medioambiental de los consumidores y los derechos laborales apoyando que en el texto final se ratifiquen los convenios fundamentales de la oit

en la posición que le fija el parlamento o que quiere fijarle el parlamento a la comisión negociadora tampoco se han olvidado los parlamentarios socialistas europeos de la defensa de los productos agrarios especialmente sensibles y ahora sí vamos ha sido notorio

incluso una vez votado el dictamen sobre quién debe resolver en caso de diferencias entre los inversores y los estados en el dictamen se habla de jueces independientes yo también estoy de acuerdo que esto no concreta demasiado nosotros también somos partidarios de que los tribunales ordinarios de cada país sean los que dictaminen por eso el dictamen entre otras cosas

se devuelve a la comisión de comercio internacional para que vuelva

corregirse estas cuestiones esto es lo que se va a hacer esto es lo que se ha decidido bien en conclusión

en general las directrices del dictamen que elaboró la comisión el pasado día veintiocho todos los socialistas europeos deseamos que la propuesta que ofrezca la comisión al parlamento europeo para esa ratificación sea digna de nuestro apoyo

que el voto socialista solo se emitirá una vez conocido y ser aceptado

entonces podrá contar con el apoyo socialista o no quedan bastantes hitos

y para que se tomen decisiones mientras tanto señor matute

sobre un asunto sencillo y cercano y no nos quiera colar de matute en minúscula con una

responde a las siglas en inglés de la asociación transatlántico para el comercio y la inversión

que la unión europea está negociando con estados unidos el diecisiete de junio de dos mil trece el consejo de la unión europea aprobó el mandato por el cual se autorizó

con estados unidos no fue hasta el nueve de octubre de dos mil catorce cuando el documento con las líneas negociadoras de la unión europea fue publicado

y acusaciones de secretismo opacidad y falta de transparencia absolutamente justificadas las negociaciones las están llevando a cabo la comisión europea

de estados unidos el mandato de negociación tiene por objetivo alcanzar sobre acceso al mercado cooperación regulatoria y normativa el parlamento europeo no participa en las negociaciones pero los tratados le confieren la potestad última de aprobar o no el acuerdo es decir el parlamento europeo tendría en última instancia derecho de veto el parlamento

verde al acuerdo las negociaciones siguen su curso

no está cerrado es decir de momento no hay acuerdo por lo tanto lo primero que deberíamos decir claramente es que es imposible votar una consulta sobre un acuerdo que no existe el veintiocho de mayo de este año la comisión parlamentaria de comercio internacional

dicha resolución lo que hace es señalar lo que a juicio de la eurocámara deberían ser las prioridades y los límites de la comisión a la hora de negociar la resolución fue aprobada con veintiocho votos a favor y trece en contra upyd no participó en la votación al no tener representación en esa comisión

el pleno la resolución tendría que haberse debatido y votado ayer y esa resolución habla de transparencia

permitiría que más documentos fueran accesibles y que el debate público sea posible cosa que de momento pues no ha ocurrido upyd ha mostrado un compromiso inequívoco con la transparencia en estas negociaciones nuestra jefa de delegación en el parlamento europeo

pidió a la comisión traducir todos los documentos desclasificados a las distintas lenguas oficiales de la unión como primer paso hacia una mayor apertura del proceso

permanentemente la máxima transparencia posible en todos los trámites diálogos y negociaciones segundo punto acceso a nuevos mercados

en particular y que deben establecerse en una lista exhaustiva además la resolución pide que se incorpore una cláusula de salvaguarda que pueda ser

a la producción europea también se piden importantes salvaguardas para el sistema de indicaciones geográficas de la unión europea otro punto servicios

de los servicios públicos como sanidad educación o abastecimiento de agua del acuerdo comercial el texto que se votaría hace referencia a dicha exclusión y deja claro

las que tengan plenas competencias en relación a la cooperación reglamentaria la cooperación en materia reglamentaria tiene un importante papel a la hora de reducir

a pequeñas y medianas empresas no obstante hay normativas que bajo ningún concepto rebajadas en este sentido la resolución es contundente al señalar que no se rebajarán las normas sobre trabajo salud y seguridad así como los estándares ambientales en relación a los estándares los estándares europeos deben mantenerse en un capítulo específico sobre sostenibilidad

con el miedo a que los estándares laborales puedan verse mermados y es que los estados unidos no han ratificado seis de los ocho principales convenios de la oit entre ellos los que conciernen a la libertad sindical y a la negociación colectiva

dentro del acuerdo un capítulo sobre desarrollo sostenible que sea vinculante y ejecutable el documento establece que no habrá tampoco negociación sobre transgénicos

animales con fines agrícolas o productos tóxicos en todos los acuerdos de libre comercio se contemplan mecanismos para resolver los problemas que puedan derivar

de defender a los inversores y a las empresas que tienen sobre el papel menor poder que los estados sin embargo también es necesario asegurar que estos mecanismos no afecten directamente

hace referencia precisamente a la protección de los derechos de los inversores el isds es el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados se trata de un mecanismo generalmente de arbitraje existente en numerosos acuerdos comerciales de toda índole la comisión europea propone introducir mejoras en el isds

de los jueces y un mecanismo de apelación y en el medio plazo la creación de una corte internacional de inversiones como base para las negociaciones sobre un nuevo y eficaz sistema de protección de la inversión que sustituya al isds hace referencia a los sistemas jurídicos de la unión europea y de los estados unidos y a dicha propuesta como solución permanente para la resolución de disputas entre inversores esto es porque las leyes han de ser hechas por los parlamentos que son la representación de la voluntad popular y han de ser ejecutadas por jueces y magistrados que representan al poder judicial

de controversias proteja a los inversores pero que no sirva como trampilla para afectar a la legislación de los estados sin pasar por los necesarios controles democráticos upyd ha mostrado su convencimiento de que ha de existir un mecanismo que proteja a los inversores sin embargo el mecanismo de arbitraje presente en otros acuerdos no satisface el nivel de exigencia

upyd apuesta por impulsar un sistema evolucionado y revolucionario más transparente y democrático la propuesta de la comisaria es un pequeño avance aunque

ha enmendado activamente opiniones de otras comisiones parlamentarias sobre el ttip tanto maite pagazaurtundua como beatriz becerra han solicitado

los estándares europeos que se facilite el acceso a los documentos ya clasificados con su traducción que se garantice que es el tribunal de justicia de la unión europea

y alternativas al isds también hemos pedido incluir una referencia de desarrollo en el acuerdo y que la comisión evalúe sus implicaciones finalmente upyd quiere que se tomen en consideración las aportaciones realizadas por la defensora del pueblo europeo sobre la cuestión en la justificación de la iniciativa de eh bildu habla de que el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión entre estados unidos y europa se puede convertir

las últimas décadas y su preocupación es entendible nosotros efectivamente no queremos que se convierta en un pacto que pueda llegar a ser negativo para el conjunto

la información que nos llega es escasa y esto también es cierto

escasa y también se dice en esta justificación que el acuerdo no beneficia en absoluto a la sociedad ya que va a suponer un recorte de los derechos de las personas y una precarización

dos cosas por un lado que de momento no hay acuerdo y que precisamente lo que nosotros queremos evitar es precisamente eso que eh bildu plantea como amenaza es decir no queremos que ese acuerdo perjudique a la sociedad no queremos que ese acuerdo en caso de que se produzca suponga un recorte de los derechos de las personas

suponga una precarización de los derechos de los trabajadores

de la máxima información posible y de la máxima transparencia posible es así y lo venimos reclamando no es que sea importante es que es fundamental disponer de la máxima transparencia y de la máxima información y de la máxima participación

para los ciudadanos a partir de ahí propone una consulta que no puede plantearse porque ese acuerdo no existe nosotros lo que queremos pueda producirse la máxima información posible que haya la máxima transparencia posible que los ciudadanos puedan participar puedan conocer puedan saber cosa que durante

no ha sido posible esto era lo que nosotros reclamábamos en nuestra enmienda de totalidad

supeditar cualquier ratificación o asociación al menos al respeto íntegro de la normativa y estándares europeos de protección de los consumidores y de sus derechos

irrenunciable la protección de los intereses sociales de los ciudadanos antes que

agentes económicos y esto es básicamente lo que recoge la enmienda de transacción que finalmente hemos firmado con el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos de todo esto habla de transparencia de participación de información de que se cumplan una serie de

se pospuso esa votación y ese debate nuestra primera idea era votar en contra de esto que se debatía ayer pero finalmente
no se ha debatido eskerrik asko maneiro jauna termino en todo caso queremos que si se llega a producir

acuerdo sea útil y beneficioso para el conjunto de la sociedad creo que la posición es perfectamente clara gracias eskerrik asko maneiro jauna

que implican esas cifras pero desde luego cualquiera de los militantes o simpatizantes de eh bildu que animaba a participar en las convocatorias

la intervención de una diputada de amaiur en el congreso de los diputados se tuvo que sentir yo creo muy pero que muy arrepentido

a esas manifestaciones decía así he entresacado algunas frases entrecomilladas y textuales el mayor ataque a la democracia desde la segunda guerra mundial el secuestro y ataque a la soberanía política y económica de los estados

supongo que la edificación se refiere al modelo europeo de bienestar social lograda tras años de lucha ciudadana y de los trabajadores y de las trabajadoras y otra más

al principio de prevención europeo sin condicionantes sanitarios ni control previo o sea comida basura para todo el mundo

yo con lo de la comida basura para todo el mundo dejo de

me interpone una reclamación arbitral internacional por derechos de autor y lo de internacional lo digo porque el discurso lo hizo en madrid

con la propuesta que hoy planteaba teníamos la posibilidad de enmendar el error cometido en aquel debate tengo aquí la transcripción del debate y simplemente voy a leerle el último párrafo de la intervención de nuestro diputado señor azpiazu que dice de todas formas existen riesgos señora aristegi es cierto son reales y hay que tratar de evitarlos a toda costa por eso precisamente es bueno poner luz y taquígrafo sobre la negociación

y establecer los mecanismos de participación de forma que el acuerdo sea el de todos y no responsa solo a los intereses de los poderosos consideramos en el grupo vasco que esencialmente

y los votaremos favorablemente en cualquier caso aristegi andreak esaten zituen hori eta gauza horien

todo ello solo tiene un objetivo producir producir mejor y consecuentemente colocar el producto producido en el mercado porque sin mercado no hace falta producto ni empresa ni trabajador ahora cómo hay que hacerlo pues bien

estábamos de acuerdo en términos generales con el documento de recomendaciones que se iba a votar ayer en el parlamento europeo y que no se votó

estamos de acuerdo con que el objetivo principal tiene que se facilitar el acceso a ese mercado del que hemos hablado a las pymes porque digan ustedes lo que digan las grandes transnacionales esas

acceden a todos los mercados y reclaman sus intereses contra cualquier estado desde hace muchos

por cierto por si no lo saben en este momento el estado al que pertenecemos tiene en su contra quince reclamaciones en el ciadi que es la instancia arbitral del banco mundial

estamos de acuerdo con instar a la comisión a ratificar las convenciones de la oit y a vetar el social con la aplicación del principio de prevención sanitaria

con las cláusulas de exclusión de los servicios públicos con la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales con la ratificación de los acuerdos en materia ambiental etcétera etcétera estábamos de acuerdo en términos generales con las recomendaciones del documento que se iba a votar ayer y que no se votó y si el posponer la votación tiene como consecuencia que el documento se mejore pues nosotros más de acuerdo estaremos aún el documento mejorado en todo caso no está de más recordar que el tratado que negocia la comisión solo entrará en vigor una vez aprobado primero por el consejo europeo después por el parlamento europeo si no me equivoco ese mismo parlamento que ayer decidió retrasar la votación de las recomendaciones y que luego además veintiocho parlamentos